gracias señora presidenta señorías buenas tardes el agua residual y su reutilización este es el lema elegido por la asamblea de naciones unidas para la celebración del día del agua el veintidós de marzo

dos mil diecisiete se nos olvida muy a menudo que pertenecemos a un país españa desarrollado

lo que se produce cada día en nuestros hogares tener suministro de agua potable de calidad es un gran logro social

a las que no les llega agua potable de calidad además contamos con sistemas de saneamiento de recogida y tratamiento de aguas residuales sistemas que no llegan

el cambio climático sus efectos y los recortes en los fondos para la cooperación no han ayudado a mejorar la situación a nivel mundial

de aguas depuradas se viene realizando desde hace varias décadas es en el real decreto ochocientos cuarenta y nueve barra ochenta y seis

del dominio público hidráulico dedicados a la reutilización de las aguas depuradas de acuerdo con el mandato de la ley general de sanidad del mismo año

en la mencionada ley y que no es otro que las administraciones competentes en materia de agua deben participar en este ámbito

vigilancia la promoción y la mejora de los sistemas que permiten alcanzar parámetros de calidad de aguas compatibles con la salud de la población a esta legislación le han sucedido otras modificaciones siempre con el objetivo de mejorar esta práctica su gestión

y extender el modelo al resto de europa de tal manera que la gestión y reutilización de las aguas depuradas

del segundo ciclo dos mil quince dos mil veintiuno y durante el año dos mil dieciséis el ministerio de agricultura alimentación y medio ambiente junto con la comisión europea y malta han trabajado en un grupo sobre reutilización de agua para diseñar estrategias que permitan incrementar la eficacia del uso de los recursos además de los requerimientos mínimos de calidad que se exigirán a estas aguas y con objetivo de elaborar una guía europea

y para qué podemos usar estas aguas o podemos destinar estas aguas depuradas y que ya está regulado de alguna manera para uso urbano residencial riegos de jardines privados

para servicios el riegos de zonas verdes urbanas la limpieza de calles el lavado de coches

para el uso agrícola los pastos la acuicultura regadíos

viveros forrajes en vitoria tenemos un ejemplo muy interesante sobre este sistema de riego con aguas

pero también para uso industrial para aguas de proceso y limpieza para torres de refrigeración

en españa en muchos puntos para uso ambiental para recarga de acuíferos para

zonas verdes mantenimiento de humedales o de caudales mínimos etcétera cada persona utilizamos aproximadamente

el tratamiento y la reutilización de las aguas residuales es una forma de abordar la escasez de agua extender el ciclo de vida del agua y preservar los recursos

de medio ambiente asunto marítimos y pesca que para la economía circular

en la reutilización de las aguas municipales tratadas esta reutilización también puede ser una oportunidad económica que las empresas de la unión europea pueden aprovechar ayudando a crear empleos y oportunidades

en el medio ambiente desde la comisión europea se impulsa y se promueve más aún

en agricultura principalmente y recarga de acuíferos esta reutilización del agua y su destino a la agricultura supone un beneficio importante se puede mantener el volumen de hectáreas en regadío y garantizar este suministro

reduciendo el riesgo de malas cosechas y pérdidas de ingresos por falta de agua también supone un impacto en positivo en el valor de la tierra permite dar valor a las tierras de secano en araba como les decía antes tenemos un ejemplo muy interesante la estación de aguas residuales y reutilizadas en arrato

en mil novecientos noventa y cuatro con una inversión de cuatrocientos millónes de pesetas se reutiliza un cincuenta de lo que se depura en treinta mil metros cúbicos que se dedican a regadío regadío

del ayuntamiento de vitoria y es un ejemplo que también ha sido reconocido por unesco por lo tanto modelos hay y

trabajando en este área por ejemplo nos decían desde el consorcio de aguas de rioja alavesa que sería interesante la reutilización porque ellos tienen preocupación por la escasez de recursos hídricos por los problemas de abastecimiento en algunas zonas porque se podía utilizar para el uso moderado de jardines públicos también de jardines privados

para el control de las huertas en definitiva creo que la reutilización de las aguas depuradas es necesario

es el objeto de presentar nuestra iniciativa nuestro grupo presentó una iniciativa

presentaron enmiendas hemos llegado a una enmienda de transacción que votaremos a favor los grupos del gobierno y el grupo popular y creo que el resto se van a abstener pero en cualquier caso me parece una postura muy positiva esta iniciativa porque

la reutilización de las aguas depuradas porque hay quien ante la escasez de agua propone reducir

y lo que tenemos que conseguir es abordar esto desde una manera integral y utilizar la reutilización como

y los estados miembros la enmienda de transacción a la que hemos llegado dice así el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que en coordinación con el resto de organismos e instituciones competentes en la gestión de agua en el país vasco se impulsen y se desarrollen los planes existentes que contemplan la implantación de sistemas de reutilización de aguas

de agua de manera segura y eficiente especialmente mediante la realización de los necesarios estudios de viabilidad técnica económica de la reutilización de aguas

incentivadoras a los usuarios como les decía estas medidas están recogidas en los planes hidrológicos pero es verdad que hay que ponerlas

de cómo podemos aplicarlo ya aquí estamos en el dos mil diecisiete estos planes son del dos mil veintiuno por lo tanto lo que décimos en este punto es

se activen medidas incentivadoras para que aquellos sistemas que están en marcha

se modifiquen las cuestiones que haya que modificar para que estén plenamente

a la idea europea o a la guía de buenas prácticas que se está haciendo desde europa y que

en el segundo punto décimos que el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que en coordinación con los organismos e instituciones competentes en la gestión del agua en el país vasco

las mejoras necesarias de adaptación a las exigencias de la normativa europea de la materia para los titulares de los sistemas de reutilización de aguas residuales que están funcionando en el país vasco se están haciendo infraestructuras nuevas de depuración modernas

de si esas aguas depuradas pueden ser reutilizadas

pero creo que es un momento oportuno para potenciar estos sistemas de reutilización

muy singular que ya lo he dicho más veces en esta cámara hablando del agua pero es que la parte seca del país vasco suministra de agua a la parte húmeda esto es curioso

van a tener problemas con el suministro de agua potable qué pasa tendremos que pensar qué hacer para que

garanticemos que no pasen estas circunstancias porque en un periodo de

y hoy esos sistemas no los tenemos hace unos años cuando hubo una sequía se hicieron unas tuberías de conducción para enlazar

agua de otros sistemas de suministro pero es que hoy

y están totalmente destrozadas si mañana hay que hacer o hay una dificultad para dar agua potable a toda la población

que hicimos en su día que no se ha mantenido está destruida porque no ha habido mantenimiento por lo tanto señorías

pero muy en serio es nuestra base de funcionamiento y por lo tanto creo que además

en condiciones tenemos que pensar que si podemos aprovechar el agua depurada y la podemos reutilizar

pero no tenemos buena distribución aquí como les decía la parte seca del país vasco suministra de agua a la parte húmeda esto dicho así pues yo creo que es para hacernos pensar que algo no estamos haciendo bien

arratsalde on guztioi coincido con la señora lópez de ocariz en que el tema del agua es muy serio y que requiere una reflexión profunda

lógicamente le reconozco el mérito de haber presentado esta iniciativa y además

que aunque está muy de moda en ciertos ámbitos necesita aterrizarse también en este del agua sin embargo más allá del agradecimiento una vez que vimos la proposición que nos hacía que es una propuesta correcta desde el punto de vista teórico nos ha generado dudas desde el punto de vista práctico por qué

los países que ahora mismo están abordando el tema de la reutilización de aguas residuales son países con una escasez de recursos hídricos

incluso en regiones como murcia pero no están en la misma situación que euskadi y por otra parte

y es cierto que la unión europea recomienda reutilizar el agua pero no solamente las aguas residuales sino otros tipos de agua también

hay que adecuar la calidad de ese agua al tipo de uso que se pretende dar para no utilizar pues agua potable por ejemplo para riego de calles como se está haciendo

de lo que es hoy en día la situación de las aguas residuales en euskadi en primer lugar de la escasez o no de recursos hídricos y yo le diría que en euskadi a día de hoy no debería de faltarnos el agua

mal gestionada está mal gestionada y posiblemente incluso hasta mal repartida

por un lado usamos más agua de la que necesitamos realmente por otro lado y ya se demostró en el debate de la semana pasada no depuramos la que usamos o la depuramos mal o incluso las infraestructuras de depuración no funcionan correctamente y en resumen lo que tenemos es que somos poco eficientes en el uso del agua y entonces

hay muy pocas campañas a día de hoy que hagan referencia al ahorro y aún menos en el sector agrícola que como usted ha dicho es el que a día de hoy empieza a tener mayores dificultades o en el que le puede ver un poco

hay pocas campañas de ahorro las tarifas del agua son bajas la unión europea dice que el estado español no cubre los costes del servicio y claro

y una fiscalidad insuficiente porque el canon del agua que se aplica en euskadi no es universal hay sectores que no pagan el canon del agua entre ellos también el sector agrícola

no tenemos una tendencia a ahorrar agua y esto sí es un problema importante eso sí es un problema importante si a día de hoy nuestro consumo de agua en el ámbito urbano e industrial fuera menor tanto en la capital como posiblemente en el gran bilbao

sería muy positivo señora lópez de ocariz posiblemente la curva de garantía de los pantanos tendría que ser menor

que no solamente debemos de mirar a reutilizar agua sino que también el ahorro de agua posiblemente podría tener un efecto positivo también en los regadíos no es una cuestión como dice usted de que haya menos regadíos y de que haya menos industria sino de que esos regadíos y esas industrias

y respecto al agua mal depurada pues claro es el segundo problema que tenemos en euskadi las consecuencias ya lo dije la semana pasada de no invertir en infraestructuras de depuración

y una afectación a la economía en forma de menos agua para regadío y de peores cosechas claro

residual de mala calidad mal depurada la propuesta que hace usted pierde parte de su sentido por qué porque los usos del agua reutilizada por ejemplo para el regadío de cosechas para consumo humano es muy problemático tan problemático como que puede llevar consecuencias de bacterias virus presencia de antibióticos metales pesados o como se ha visto en las aguas

donde dice que antes de proceder a la reutilización de aguas residuales

el panorama que planteamos la semana pasada de que las aguas residuales vascas en muchas ocasiones están mal depuradas entonces ahí tenemos un primer problema importante

hay usos que son interesantes como el río de zonas urbanas o el uso de instalaciones contra incendios pero vuelvo a lo mismo si tenemos un agua de mala calidad

y podríamos utilizarla para otros usos menos interesantes en euskadi como podría ser el riego de plantaciones forestales o la recarga de los acuíferos pero a día de hoy reitero que en euskadi no es una cuestión no son cuestiones digamos de importancia capital que sí pueden ser en otros países o en otros lugares con un mayor estrés

es que tenemos un tipo de agua en euskadi que sí podríamos reutilizar que es el agua fluvial las aguas fluviales

sobre todo en la parte húmeda de euskadi y tenemos una opción ahí de reutilizar aguas

residuales de las depuradoras y de ahí que nuestra enmienda fuera en ese sentido claro para poder utilizar esas aguas residuales necesitamos

potentes similares al que usted plantea para las aguas residuales pero de mayor alcance incluso se necesitan desarrollar por ejemplo redes separativas de aguas fluviales y aguas residuales

tenemos que desarrollar sistemas para aprovechar los excedentes que pueda ver en albercas o en tanques de tormentas que por ejemplo en la vertiente cantábrica se están popularizando bastante

el gobierno de la rioja hizo un informe de que en sus redes de abastecimiento están desperdiciando el cuarenta y ocho por ciento del agua

lo dice el gobierno de la rioja pues posiblemente en la rioja alavesa a lo mejor hay que hacer un estudio similar de hecho hay una auditoría pero he sido incapaz de encontrar el resultado de esa auditoría qué quiere decir esto que tenemos que hacer muchas otras cosas antes de hacer

convenientemente tenemos por lo tanto que depurar completamente las aguas residuales antes de proceder a esta reutilización y tenemos también tengo que decirlo aquí orientar la modernización de los regadíos también de los regadíos alaveses al uso eficiente del agua no hay que modernizar

específicamente orientar esa modernización al uso eficiente del agua en conclusión aunque vemos que su propuesta es interesante sí creemos que yerra

lo cual no quiere decir que nos opongamos de hecho nuestra postura va a ser la de abstenernos a la enmienda transaccional

tiene debería de tener mayor importancia y mayor peso a día de hoy nada más muchas gracias eskerrik asko becerra jauna

gracias presidenta y buenas tardes a todos efectivamente el tema de la reutilización del agua que hoy nos plantea la señora lópez de ocariz escuchando a algún portavoz

ya se hacía y desde luego se hará que efectivamente son técnicas que se pueden mejorar probablemente

planteando el tema como si fuera algo nuevo dentro de la administración incluso

del departamento del gobierno sino que los ayuntamientos también tienen mucho que decir

usted ha hablado señor becerra de campañas de ahorro creo que se hacen ha hablado del tema de las tarifas del agua incluso ha nombrado el tema del canon del agua y es uno de esos temas en el que se está muy de acuerdo cuando hablamos en la tribuna o en cuando escribimos documentos sobre el papel pero a la hora de pactar el canon del agua me gustaría que pudiera leer todas las actas de las sesiones cuando aprobamos la ley del agua todo lo que supuso la aprobación de un canon puesto que solo había dos grupos políticos que queríamos ese canon del agua

que es el motivo por el cual estamos todavía como estamos porque el canon del agua está muy bien se marcan niveles mínimos y depende del uso que hagan las empresas o los ciudadanos pero a la hora de ponerlos en marcha efectivamente

en la ley que aprobamos en este parlamento también nos hablaba de fugas de abastecimiento es verdad pero también es justo decir que no todos hacen igual hay administraciones que han hecho grandes inversiones para evitar las fugas de agua en lo que tiene que ver con el abastecimiento y hay otros que han mirado para otro lado

teniendo mucho más presupuesto el que tiene fugas que el que abastece por lo tanto creo que también es un tema muy complejo

implicados y que creo que desde luego da mucho para hablar y para debatir y como decía la reutilización del agua tal y como lo plantea hoy la señora lópez de ocariz es uno de esos asuntos que

en los que por el tema del cambio climático hablamos de la sequía incluso también podemos hablar en ocasiones de aguas torrenciales que la tierra es incapaz de absorber y que también generan problemas hay planes hidrológicos que afectan al país vasco en lo que tiene que ver con este tema como son el plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del cantábrico

el plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del cantábrico occidental elaborado por la confederación hidrográfica del cantábrico el plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del ebro y todos ellos han sido revisados recientemente

por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos por eso a veces cuando se habla de la necesidad de elaboración de nuevos planes no hace falta hacer nuevos planes porque los planes están hechos lo que hay que hacer es

la reutilizaciones más significativas en el país vasco en la actualidad no es una ni dos

las más significativas son por ejemplo la comunidad de regantes de arrato en álava que reutiliza aguas residuales de la edar de crispijana con destino a una zona regable

cuatro hectómetros cúbicos al año por lo tanto es muchísimo sí se reutiliza petronor

reutiliza e incorpora posteriormente al proceso de agua procedente de la planta de tratamiento de aguas residuales industriales de baja salinidad el consorcio de aguas de bilbao bizkaia reutiliza parte del vertido de la depuradora

de valoración energética de lodos de depuración también hay que destacar el bombeo que durante los meses de estiaje se realiza desde el efluente del alto urola aguas arriba por lo tanto en euskadi sí que se reutiliza el agua y el ayuntamiento de vitoria que tengo que decir que es uno de los ayuntamientos que más inversiones ha hecho para evitar fugas para que las instalaciones estén como tienen que estar y ha ido por delante de ayuntamientos con un presupuesto muchísimo mayor reutiliza aguas residuales de la edar de crispijana para baldeo y riego de jardines con una cifra estimada para la actualidad

cúbicos al año por lo tanto creo que efectivamente se puede mejorar y debemos mejorar puesto que

la sequía que otras comunidades autónomas sufren más que euskadi y desde luego convendría que actuáramos sobre ellos en el plan hidrológico del cantábrico oriental la reutilización se aborda el plan de actuaciones está enfocado al fomento de la reutilización de las aguas residuales en aquellos procesos compatibles con su calidad

puedan sustituir el recurso hídrico convencional por agua reutilizada porque se entiende

y efectivamente convendría que reutilizaran probablemente los niveles que ya tienen pudieran superarlos en el plan hidrológico del ebro la reutilización se aborda de una forma más general en él se hace referencia a la conveniencia de impulsar

normativa en el programa de medidas no hay previsiones concretas de incremento significativo de la reutilización de aguas residuales para el territorio de álava

determinadas iniciativas concretas porque sí que las hubo para el uso de aguas residuales

sino que hay que poner en marcha unas nuevas más ajustadas a los tiempos en ese sentido en relación con la reutilización para usos de regadío las administraciones agrarias del país vasco incluyendo el gobierno y la diputación foral de álava

un planteamiento que apuesta fundamentalmente por una agricultura de mayor calidad estas administraciones han considerado que este planteamiento quizá compatible con la utilización de aguas regeneradas como origen del riego en consecuencia los últimos planes de mejora de regadíos apuestan no por el incremento significativo de la reutilización sino por la regulación de escorrentías invernales

esto yo creo que es un tema más técnico que otra cosa yo lo único que pretendía era decir que la administración lleva trabajando en estos temas en euskadi muchísimo tiempo

que hay que abordar la eficacia y el ahorro en el tema de agua darnos cuenta que es un recurso natural finito cada vez más

pero también es cierto que cuando hemos intentado poner en marcha desde las administraciones algunas herramientas

y por eso le decía al principio que el canon del agua tuvo más problemas luego de los que parecía en el inicio como conclusión

la planificación de iniciativas y infraestructuras de reutilización de aguas residuales urbanas está ya realizada y se encuentra en los planes hidrológicos que afectan al territorio histórico de álava es decir los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del cantábrico oriental y del ebro ambos revisados recientemente y promulgados mediante el decreto antes citado por el que se aprueba la revisión

hidrográficas del cantábrico occidental entre otros aunque afecta a muchos más y la segunda conclusión es que en cuanto al estudio para la mejora o adaptación de sistemas de reutilización ya existentes

que están recogidos en las tres propuestas de los grupos parlamentarios que participábamos

y de acuerdo con los primeros que emanan del artículo nueve deben ser abordados por el titular de la instalación

sobre algunos puntos pero realmente quien tiene que actuar en este caso es el titular propio de la instalación otra cosa que desde el gobierno vasco se creen

pero efectivamente cuando uno es dueño de una instalación debe actuar sobre ella de acuerdo con la relación de instalaciones anteriormente comentada se considera que en la práctica

que probablemente es una de las preocupaciones que tenía la señora lópez de ocáriz y que desde luego entendemos que es uno de los que sí utiliza agua ya utilizada aunque coincide tanto con la señora lópez de ocáriz como el señor becerra

probablemente hacen falta inversiones para poder llevar esto a cabo porque es verdad que al final el papel lo aguanta todo y es el motivo por el que

es complicado llegar a una solución nada más muchas gracias

quiero comenzar afirmando que la filosofía que impregna el concepto de la economía circular va avanzando prácticamente en todos los ámbitos y todas las políticas públicas

que es el uso de las aguas de las afluentes de la

en nuestro país para principalmente riego agrícola y regadío de parques público que es para lo que se dedica más del ochenta por ciento de esta agua

la clave por las que pasan estas políticas tal y como he mencionado anteriormente son estas edar estas estaciones de depuración que tenemos en euskadi quisiera comentar

suministrar agua al exterior sino que se puede dar en dos casos más y se da en dos casos más una de ellas es que las aguas que se depuran son reutilizadas en el mismo proceso dentro de la depuradora y la segunda es que

decantación que se produce es utilizada para producir energía por ejemplo que hace funcionar la depuradora de galindo de sestao que es autosuficiente

con el gobierno ya tiene planes establecidos para ahondar en la reutilización del agua tal y como hemos dejado patente en la transaccional

enmienda inicial situando estas políticas en el contexto vasco y la voy a situar en contexto vasco porque quizá anteriormente

en parte diferente al nuestro el objetivo último

para el regadío por tres cuestiones que todo el mundo va a entender en primer lugar el balance hídrico de nuestro país no es ni comparable con otras latitudes no es comparable por ejemplo con murcia

con andalucía porque tenemos un clima para bien o para mal lluvioso

de este recurso es relativamente moderado señor becerra estamos en línea de la unión europea unos ciento veinticinco litros por ciudadanos

que es también responsable salvo que el clima cambie

por el momento los recursos hídricos que tenemos a nivel de euskadi son suficientes en tercer lugar yo quisiera

que alcance las óptimas condiciones para su reutilización es decir que se produzca la sedimentación el filtrado etcétera es muy caro y medioambientalmente

teniendo en cuenta los métodos mecánicos y los tratamientos químicos que les hace falta yo me alegro

reutilizar es ecológico y es bueno y no reutilizar es ecológicamente reprobable porque precisamente el reutilizar agua cuando existen

es precisamente muy poco ecológico por lo tanto me alegro de que en este caso tanto el señor becerra como en menor medida la señora lópez de ocáriz hayan dibujado un escenario bastante correcto

la reutilización del agua hay que estudiarla caso por caso como solicitamos en la transaccional y tal y como el gobierno

ya le he dicho ya le he comentado a la señora lópez de ocariz que

más válido para el sur de españa donde los recursos hídricos no son tan abundantes como aquí con el

en lo que tiene que ver con la eficiencia ya le he dicho que

estamos en la media de consumo de la unión europea tenemos ejemplos de éxito en cuanto a eficiencia en cuanto al uso del agua como se ha mencionado también petronor

de regadío para gran parte de álava y yo personalmente el domingo me dediqué un poquitín a ver por

existentes de ahorro de agua y de eficiencia y yo les

solo me suenan dos campos de golf en euskadi el de artxanda y el de

de fuera no de estar dentro y los googleé puse

agua y la primera entrada era la del boletín oficial del país vasco

que hablaba de las medidas que deben tomar el campo de golf citado

literalmente porque más exigente y más eficiente no puede ser es decir medidas relativas al consumo y gestión de agua de acuerdo con la documentación presentada por el promotor en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y sin prejuicio de lo que en su caso establezca el órgano competente en materia de aguas

de las aguas de escorrentía y drenaje del campo de golf y de las aguas procedentes de los sistemas de depuración de aguas residuales previstas en las instalaciones cualquier otra procedencia del agua riego deberá contar con la aprobación previa por parte de la viceconsejería

y esto ocurre en un país que tiene suficientes recursos hídricos que tenemos que aprovechar ahondar en la eficiencia tal y como ha mencionado la señora rojo y

en un texto transaccional que tiene visos de racionalidad eskerrik asko

badagoela y hablo de una comunicación de la comisión al parlamento europeo y al consejo del año dos mil siete

y hablaba de que las regiones donde todas las medidas de prevención se han implementado de acuerdo con la jerarquía del agua el ahorro de agua política de precios soluciones alternativas eficiencia y teniendo debidamente en cuenta la dimensión coste beneficio y donde la demanda aún excede la disponibilidad de agua en algunas circunstancias las nuevas infraestructuras se identifican como una posible

la reutilización de aguas residuales se consideran cada vez más como soluciones potenciales en toda europa

gero ez dut ulertzen de acuerdo con la propuesta de la unión europea de reutilización de agua de manera segura y eficiente

gero esaten da baita ere eventuales medidas incentivadoras a los usuarios

y de las mejoras necesarias de adaptación a las exigencias de la normativa europea en la materia

hemen daukat el mil seiscientos veinte barra dos mil siete por el que ese establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas ba

errege dekretu honek bueno es que inglesez dago vaya lio

más rigurosas en la actual irrigación de la agricultura que son más exigentes

aurrekoetxea le tengo que hacer una advertencia creo que la sierra de grazalema es la zona de españa donde más llueve y eso está en cádiz

la ciudad que mejor calidad de agua tiene es burgos y ambas dos están en españa ya sé que usted ha mostrado aquí unos perjuicios porque he dicho españa no se agobie no

en una comunidad autónoma que forma parte de españa y parte de europa y

pero gracias por llegar a colaborar

señor becerra le entiendo perfectamente cuando usted me habla de las pluviales y todos somos conscientes de que es una exigencia que a la hora de renovar las redes de agua tanto de abastecimiento saneamiento y pluviales y eso ya lleva muchísimos años que se tiene que aplicar así

lo que van es directamente a los caudales de los ríos y lo que hacen es mantener el caudal del río no van a la depuradora de manera que no cargamos la depuradora con el agua de pluviales

de alto estrés hídrico por lo tanto creo que

nos parece interesante que centremos la atención en las aguas residuales

para esos usos que les vamos a dar después además las aguas residuales

dependiendo de cómo caiga la red por lo tanto habría que hacer una red de recogida de las pluviales para poder llevarlas

yo no le digo que no sea interesante pero igual en este momento nos parece

más urgente por así decirlo el centrarnos en las aguas residuales

el tratamiento de las aguas depuradas

conforme con la ley de sanidad del momento por lo tanto bueno tiene su coste y efectivamente como le decía

a separar los dos conceptos pero yo entiendo que en zonas de efectivamente es un agua a tener en cuenta para reutilizarla sin ninguna duda

las medidas de reutilización del agua están en los segundos planes que son los que van del dos mil quince al dos mil veintiuno antes hemos tenido el que iba hasta el dos mil quince y luego vendrá el dos mil veintiuno dos mil veintisiete esta medidas están aquí es verdad que estos textos

dispersas con lo cual nuestra idea era fijar eso en un documento ágil

manejar con cierta soltura y además planificar las prioridades de alguna manera los planes tienen las prioridades más o menos marcadas y bueno pues el gobierno en este tema lo que ha dicho es que efectivamente nosotros apoyaremos

y el plazo dos mil veintiuno nosotros entendemos que cuanto antes se empiece a hacer porque hoy

y por lo tanto nos parece que estamos llegando a un momento que urge hacer esto lo que pedimos era una planificación

vamos a ver si somos capaces pero bueno eso al gobierno no le ha parecido prioritario y luego son los propietarios de los sistemas

medidas le decía antes y porque tuve la oportunidad de hablar con alguien del consorcio de rioja alavesa y decía efectivamente tenemos que prever situaciones de estrés hídrico que se está dando en algunos casos hay dificultades de abastecimiento en algunas zonas con lo cual si yo quito de gastar del abastecimiento de determinadas usos como puede ser el regadío o

las huertas o determinadas actividades pues tengo más agua potable para el uso diario de la población y como eso tantas otras cosas y poder regar también pero no solo es el riego

siempre he defendido el sector agrario pero hay muchos usos que son imprescindibles o sea no solo es el riego el riego es una actividad económica

le aporta muchísimo a la actividad agraria pero también hay otros usos que son necesarios y también hay industrias que son imprescindibles y utilizan bastante agua por lo tanto en todo eso es lo que tenemos que pensar y en todo es lo que nos ha animado a presentar la iniciativa yo les agradezco a ambos que tenga esta actitud

porque yo creo que estamos todos en la misma línea es verdad que a veces nos gusta ante estos mucho más concretos y mucho más ajustados y yo también quisiera y

y que se comunique y que se promocione el uso racional del agua y efectivamente en eso estamos y

la afirmación del señor arruabarrena de que no siempre la reutilización del agua es lo más ecológico

y es verdad en ocasiones en ocasiones puede resultar más caro e incluso energéticamente que no reutilizarla

pero es verdad que bueno es una opción interesante y yo se lo he reconocido a la señora lópez de ocariz

con el agua que pasa por una depuradora es echarla al cauce del cual la habíamos cogido antes pero si la necesitamos si tenemos necesidad de ella lo que yo he intentado plantear

a punto de que le gane un chupito al señor uria porque no le ha faltado nada para decir que antes que nosotros ya habían hecho más cosas y es verdad

para afearle ni nada parecido si ya sé que ustedes debatieran el canon del agua ya sé de las dificultades que hubo para aprobar el canon del agua por supuesto y lo que sí

usted ha dicho el agua es un recurso finito cierto y tenemos que asumir que es un recurso finito pero también que es un recurso valioso

las tasas de las tarifas del agua no recogen

no todos los sectores están asumiendo que ese agua tiene un precio y tiene un valor

claro usted usted dice hay una comunidad de regantes que está utilizando el agua de crispijana bueno yo

no soy experto pero teniendo en cuenta que se ha encontrado lindano en el afluente de la edar de crispijana no creo que sea ahora el uso más adecuado

para riego de cosechas lo dejo ahí quizás entonces empiezo a entender el segundo punto como decía el señor otero la necesidad de hacer un estudio de la viabilidad técnico económica y de las mejoras necesarias de adaptación a las exigencias de la normativa europea

a todo correr van a tener que ir a mejorar el sistema de depuración yo entiendo y quizás en eso voy a responder a la señora lópez de ocariz en la última cuestión la viabilidad la viabilidad de la reutilización de las aguas residuales quizás la tendríamos que ver también desde el punto de vista económico

sobre todo en la vertiente cantábrica señora lópez de ocariz porque es allí donde precisamente como usted muy bien ha dicho una parte de la vertiente cantábrica está sometiendo al sistema zadorra a una mayor presión porque la mitad de la población vasca se está abasteciendo del sistema zadorra lo que le he querido decir es si en la vertiente cantábrica mejorásemos

posiblemente de forma indirecta el sistema zadorra tendría mucha menos presión

sin necesidad de recurrir a unas aguas residuales que como ya he dicho al principio

los parámetros de calidad que necesitan nada más gracias eskerrik asko becerra jauna euskal sozialistak rojo andrea zurea da hitza

muy brevemente parece que no me quiere pagar el chupito no sé si se lo tendré que pagar yo porque efectivamente no les iba a decir eso pero es verdad

y lo único que he querido decir yo si no ya verá cuando hagan la transcripción del pleno de hoy

que probablemente se puede mejorar en las acciones que está haciendo el gobierno por supuesto que el agua es un recurso y valioso y ojalá se valorara mucho más por todos los ciudadanos en el valor que tiene y usted me habla de tasas de tarifas pero usted sabe que eso no compete al gobierno vasco

que es verdad que en esta comunidad autónoma es más barata que en otras es cierto pero una vez más le estamos pidiendo casi al gobierno que reconozca algo

en el desarrollo de sus propias competencias luego el señor otero hablaba

no le gustaba mucho ha sido más ha querido ser más benévolo de lo que yo le he entendido

a qué planes se refiere planes con mayúscula pues como le ha dicho la señora lópez de ocariz los planes son los planes hidrológicos

todos reconoceremos que aunque estemos en la comunidad autónoma vasca y estemos hablando de la política de agua del gobierno vasco reconoceremos que el agua no termina donde terminan nuestras fronteras

algo mucho más que lo que puede decir el gobierno vasco con la agencia vasca del agua a la cabeza por eso los planes hidrológicos son aquellos que ya están hechos

sino que hay que desarrollar y poner en marcha las herramientas que ya marcan los planes ya existentes y luego ha habido algo que no sé si

sobre la mesa la importancia que tiene la normativa europea las directivas europeas y todo lo que emana de europa que parece que muchas veces europa nos pone

que parece que nunca vamos a llegar a conseguir pero al mismo tiempo usted ha dicho que europa en este tema o en un tema puntual es mucho menos exigente

tenemos que llegar a la política que nos dice europa tenemos que adelantarnos

a mí lo que me parece es que nosotros tenemos una normativa de la que nos hemos dotado hay que intentar que la normativa se cumpla en tiempo y plazo como mandan las normas

y usted decía que no tenían plazos que no hay plazos marcados los plazos están en los planes hidrológicos es que todo está ahí por eso le habíamos hecho un guiño señor becerra cuando hemos puesto el tema de la viabilidad ese informe sobre viabilidad que él planteaba en su enmienda era el motivo por el cual se metía la enmienda transaccional

era un punto que aportaba y que a partir de ahí se podía mejorar el contenido de la iniciativa original que planteaba

mucho debate que probablemente seguiremos debatiéndolo la reutilización del agua es un tema que ya se está haciendo y como he dicho probablemente haya muchas cosas que mejorar que yo creo que el gobierno vasco se plantea hacerlo pero desde luego siempre teniendo en cuanta que los ayuntamientos en esto tienen mucho que decir

es responsabilidad de ellos y algunos efectivamente se tendrían que poner más las pilas nada más muchas gracias eskerrik asko rojo anderea

la señora lópez de ocariz que tengo perjuicio contra españa ninguna acabo de estar en madrid el fin de semana me lo he pasado pipa he hecho terrorismo turístico es decir he ido al centro he comido he bebido

la realidad de vallecas o sea he sido un irresponsable y me lo he pasado muy bien pero prejuicio ninguno a mí

francia etcétera sin entrar en el plano político donde ahí sí podríamos discutir otras cositas y nada más agradecerle al señor becerra el que haya mencionado mis palabras

en cualquier caso el grupo parlamentario popular sin hacer ninguna valoración política

se ha gestionado y se ha negociado la redacción y en su caso presentación

de este tipo de iniciativas sin necesidad de suspender el pleno nos parece una medida extremadamente grave suspender el pleno
creemos que si hay algún grupo que quiere impulsar un acuerdo institucional que lo haga no somos partidarios de suspender el pleno señora presidenta bale hori da zuen iritzia sí de que no somos partidarios de suspender el pleno señora presidenta bale bale ba oso ondo alderdi sozialistako

entre otras muchas medidas encaminadas todas ellas a contener el gasto público y a garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria

de julio dispuso en su artículo segundo la suspensión de la paga extraordinaria correspondiente al mes de diciembre del año dos mil doce de los empleados públicos de todas las administraciones públicas del estado se trataba de una norma básica dictada al amparo de las competencias así se invocaba las disposiciones correspondientes del real decreto ley al amparo del ciento cuarenta y nueve

como anécdota porque todo quedó finalmente en eso en pura anécdota se puede decir que este precepto decía en su apartado cuarto que las cantidades derivadas de la supresión de esta paga extra se destinarían

a hacer aportaciones a planes de pensiones o a contratos de seguros colectivos que incluyeren

así se insistía en el precepto que acabo de citar con arreglo a lo que pudieran disponer en cada caso las leyes de presupuestos

porque cuando se aprobó por parte del gobierno inmediatamente después

y participé personalmente en la sesión que tuvo lugar el día diecinueve de julio del año dos mil doce

ochenta y seis de la constitución y no creo exagerar

tanto desde el ámbito político como desde el punto de vista social y por supuesto sindical

una norma si me permite la expresión multiimpugnada

que de cuatro recursos de inconstitucionalidad y de más de treinta cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por otros tantos órganos judiciales

los recursos de inconstitucionalidad fueron interpuestos en aquel momento

que no estaban controlados por el partido del gobierno por el partido popular fue el gobierno vasco fue la junta de andalucía la

y el parlamento de navarra no el gobierno pero sí el parlamento de navarra y las treinta cuestiones de inconstitucionalidad insisto fueron planteadas pues por tantos otros órganos judiciales de en fin la más diversa ubicación en la planta territorial del estado

las cuestiones de constitucionalidad por su parte planteaban prácticamente todas ellas

la retroactividad de las normas limitativas de derechos individuales y la expropiación sin procedimiento

con aquel tribunal constitucional y en relación con un asunto como el que acabo de citar que tanta importancia tenía para el gobierno

susceptibles de prosperar era previsible o había razones fundadas para sospechar que pudieran prosperar porque

la posible vulneración de los preceptos que antes he citado y efectivamente los recursos de inconstitucionalidad fueron todos desestimados mediante sentencias dictadas entre abril de dos mil quince y junio de dos mil dieciséis solamente se salvó algún voto particular que salvó

eran inconstitucional pero por lo demás los recursos fueron todos desestimados y las

no porque el tribunal constitucional no se pronunciará sobre ellas que lo hizo sino porque dicto sentencia en todas pero sin entrar en el fondo del asunto es decir se

de constitucionalidad así lo hizo notar en una primera sentencia que se dictó en la cuestión de constitucionalidad planteada por la sala de lo social de la audiencia nacional

y después en otras treinta dictadas entre mayo de dos mil quince y marzo de dos mil dieciséis con exactamente la misma argumentación

el tribunal constitucional apreciara aquí la desaparición sobrevenida del objeto de la cuestión bueno pues es posible porque el gobierno central evidentemente

quiso anticiparse a lo que previsiblemente iba a ser una riada de sentencias desfavorables al real decreto ley veinte barra dos mil doce y para evitar esa imagen de escarnio

incluyó una disposición adicional decimosegunda en la que incluía

todavía parcial sobre la posibilidad de recuperar la paga extraordinaria suprimida en diciembre del año dos mil doce y a esa previsión en concreto se acogió

del objeto en las más insisto de treinta cuestiones de inconstitucionalidad planteadas después la proximidad de las elecciones generales del año dos mil quince

la legislatura se agotaba y en esa fecha el gobierno central tenía que dar cuenta ante la sociedad de la gestión realizada en uso de su mayoría absoluta y transformó los extremos

inmediatamente de manera sorpresiva el real decreto ley

y la ley de presupuestos generales del estado para dos mil dieciséis que se aprobó lo recuerdo el veintinueve de octubre en vísperas de la campaña electoral cuya disposición adicional decimosegunda levantaba definitivamente para el año dos mil dieciséis para el ejercicio dos mil dieciséis

sobre la paga extraordinaria del año dos mil doce como la prohibición había sido básica había tenido carácter básico su levantamiento también tenía carácter básico aunque en ese momento el tribunal el gobierno central

levantamiento de la prohibición quedaba subordinado a la situación económica o financiera que atravesase cada administración pública gauzak horrela jaurlaritzak zera erabaki zuen

han sido gestionadas por el gobierno vasco desde la máxima de intentar conciliar el obligado rigor en la gestión de las cuentas públicas con la voluntad

a irrogar a los empleados públicos es decir no evitarles el perjuicio que ya estaba provocado por la supresión de la paga extra pero sí minimizar al máximo el impacto negativo el perjuicio de esa medida en sus economías personales y familiares

ya se había hecho efectiva la suspensión de la paga extra del año

autonómico de euskadi se había aplicado por tanto ya mandato expreso del tribunal constitucional mediante el artículo segundo del real decreto ley veinte barra dos mil doce

para presentar en el mismo mes de diciembre el proyecto de ley que establecía el adelanto de las pagas extras

a lo largo del ejercicio dos mil trece de junio a enero y de diciembre

se trataba con ello de paliar el impacto negativo que la supresión de la paga extra producía en la economía personal y familiar de los empleados públicos

en la regularidad de sus percepciones económicas que tenían carácter mensual en parte pero tenían también carácter semestral en la parte correspondiente a las pagas extraordinarias en abril del año dos mil trece me tocó elevar al consejo de gobierno

al que antes he hecho referencia y tan pronto como la proximidad de las elecciones generales del año dos mil quince condujo al gobierno central a autorizar

la recuperación de la paga extraordinaria de diciembre del año dos mil doce el gobierno vasco los pagos de manera que los empleados públicos pudieran recuperar lo antes posible la cantidad que se les adeudaba pero sin que ello supusiera un quebranto de la situación económico financiera del gobierno vasco hay que recordar a este respecto que una paga extraordinaria en el sector público autonómico de euskadi

era un impacto no desdeñable precisamente y por supuesto que inasumible en aquel momento por parte de las arcas públicas por tanto se trataba de acompasar de alguna manera los pagos que existían en efectivo a las posibilidades de la situación económico financiera que atravesaban

sobre esta base el gobierno vasco en aquel momento se comprometió primero a hacer efectiva la recuperación en cuatro pagos de cuatro cuartas partes de la paga extraordinaria cuatro pagos que se iban a hacer efectivos en los años dos mil quince dos mil dieciséis dos mil diecisiete y dos mil dieciocho

se comprometía también el gobierno a adelantar el calendario de pagas así comprometido y eso es precisamente lo que hacemos con este proyecto de ley

se ha venido haciendo de manera irregular en los años dos mil quince dos mil dieciséis y dos mil diecisiete así ha venido previéndose en

pero como en este momento la situación económico financiera permite adelantar el pago correspondiente al año dos mil dieciocho lo que hacemos es adelantarlo unos meses con arreglo

en su momento de manera que se ha procurado durante todo este proceso que el impacto en las economías personales y familiares de los empleados públicos sea el menor no ha existido laguna alguna en las percepciones regulares de los ingresos por parte de los empleados públicos

han venido percibiendo una paga extra y al mismo tiempo hemos conseguido que el impacto presupuestario fuera asumible

con esto con esta medida con la propuesta en este proyecto de ley que acabo de presentar liquidamos definitivamente el asunto de la paga extraordinaria de diciembre del año dos mil doce y abrimos la posibilidad ahora sí de que a partir del año dos mil dieciocho

con arreglo a lo establecido en la legislación general de la función pública es decir en junio y en diciembre

que responden a una situación puntual que se ha hecho efectiva durante este periodo temporal entre el año dos mil doce y el año dos mil diecisiete y la aprobación de la ley

permitirá insisto dar por definitivamente

y al mismo tiempo permitirá regresar a la dinámica ordinaria prevista en la legislación de función pública para

de manera que estas se satisfarán en los meses de junio y el mes de diciembre tal y como está ya previsto en el anteproyecto de ley de presupuestos

bai yo quería intervenir en algún turno aunque no vote ni a favor ni en contra es abstención claro explicación de voto

es que no hay más pues entonces usaré el turno en contra en contra vale

la verdad es que yo también he seguido con interés la intervención del señor consejero y la evolución del artículo que citaba desde el año dos mil doce

estamos a favor de que se termine de devolver la paga extra del dos mil doce a los funcionarios del gobierno vasco

en las instituciones vascas que gobernábamos ayuntamiento de vitoria diputación de álava otros ayuntamientos porque es que el gobierno vasco es

que devuelve la extra y usted nos trae ahora una reforma de la ley de presupuestos porque ustedes en esta ley de presupuestos se limitaban a pagar el cuartillo pero decisión suya no del gobierno de españa ni de ningún otro gobierno

usted porque yo todas las semanas cuando entro al parlamento oigo una frase que dice itzarri dinero no aportado salario robado y claro es que hace ya muchos años la ley de presupuestos del estado permitía que las administraciones públicas hicieran las aportaciones ustedes

porque sus prioridades eran otras porque se gastaron el dinero de la extra en otras cosas claro y entonces ahora nos viene aquí nos ha hecho usted un discurso durante veinte minutos

suya pura y dura y yo le tengo que recordar una cosa mire once de octubre de este año

consejo vasco de finanzas acuerdo cuarto previsión de tributos concertados para el cierre del dos mil diecisiete catorce mil trescientos sesenta y siete millónes

euros hasta quinientos sesenta y tres euros es la cuantía que viene

setenta por ciento del gobierno vasco seiscientos seiscientos millónes más o menos es lo que ustedes han acordado el día once de octubre en el consejo vasco de finanzas que el gobierno vasco va a disponer de ingresos extras este año y ustedes nos traen

que falta el cuartillo que les faltaba de pagar sin un número cero números y ahora le voy a leer

afectados por la paga extra informe de la asesoría jurídica no ha incluido la memoria económica que exige la citada ley ocho barra dos mil tres

dicha modificación se sostiene financieramente sobre una modificación del estado de ingresos y de gastos

por la que se incrementa el límite de ambos oiga en este proyecto de ley que nos han traído en cuántos se incrementa el límite

en cuánto se aumenta se lo están diciendo se lo preguntan sus funcionarios

hay que explicar las cosas y hay que explicar el dinero y luego tiene otro informe porque mire que es una ley cortita de dos artículos cuatro páginas y tres informes

instada tiene un impacto económico directo que conlleva la necesidad de conocer

y concretar las variables de cálculo esto lo dicen los funcionarios que también les gustaría saber

y le dicen surge en primer lugar la necesidad de conocer la dimensión económica de la medida esto es el gasto que conlleva abordar este mismo ejercicio dos mil diecisiete hemos de remitirnos como único soporte que consta en el expediente

máxima de cuarenta y nueve millónes de euros y dicen

le apuntan la idoneidad de haber incorporado los parámetros para concluir que resulta muy complejo los demás saber cuánto ha sido y al final le dicen que hubiera sido oportuno evidenciar las cifras globales existentes en el momento mire usted nos han traído es que

que este gobierno vasco con los funcionarios les va a hacer un favor vamos a modificar la ley de presupuestos oiga es la última administración de españa no sé si queda algún ayuntamiento

gobernado por ustedes por supuesto que todavía siga sin devolver la extra a los funcionarios

y nos viene aquí a hablar el gobierno de españa modificó desde hace dos años

y aquí estamos a finales del dos mil diecisiete y voy a aceptar

dicen en la memoria a cuánto asciende después de cuando se apruebe hoy este proyecto de ley

a cuánto porque no nos lo dicen en la ley que modifican los presupuestos

no se sabe oiga y de los seiscientos millónes que acordaron ustedes porque esto lo acordaron el once de octubre consejo vasco de finanzas

y los otros quinientos cincuenta millónes de euros este parlamento tiene algo que decir tiene algo que opinar

ustedes este dinero del que vamos a disponer todos los vascos y que ustedes en un alarde de ocultación fantástica nos trae un proyecto de ley para decirnos que bueno soy que les devuelvo a los funcionarios la extra que me he negado a devolvérsela desde hace dos años

y las aportaciones a los fondos de los funcionarios hombre que yo también tengo memoria y he seguido el artículo yo me acuerdo

usted estaba en el congreso porque también recuerdo algunos diputados del pnv diciendo esto no se hace así estaba

en el congreso de los diputados porque es muy fácil decir

pero no me deja el gobierno de españa y cuando esa excusa no está

nos cuenta aquí el cuento de la lechera desde el dos mil doce dos mil trece dos mil catorce cuarenta leyes pero todavía no ha explicado por qué no devolvieron hace dos años la extra

no nos ha explicado no nos ha explicado por qué o qué van a hacer con los más de quinientos millónes de euros de los que va a disponer este gobierno

y desde luego por los que nuestro grupo exige conocer en que se va a gastar en cualquier caso señora presidenta voy a cambiar mi voto y me abstendré

sí gracias presidenta en primer lugar dar las gracias a todos por haber facilitado el cambio en el orden del día

y ya respecto al tema que nos trae aquí los socialistas vascos hemos votado favorablemente la modificación de la ley de presupuestos

del sector público de esta comunidad autónoma pudiese recuperar la totalidad de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de aquella paga correspondiente al mes de diciembre del año dos mil doce por la obligada

para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y en primer lugar hemos votado a favor porque los socialistas vascos que apoyamos en el mes de abril estos presupuestos para el ejercicio dos mil diecisiete

aquel conflicto con el personal público abierto por el gobierno español con aquel real decreto ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad

el último cuarto de la paga extra del periodo comprendido entre el uno de julio

dos mil doce que en aquel entonces se le retiró y en segundo lugar hemos votado a favor porque esta tramitación da seguridad jurídica a la decisión que ha adoptado el gobierno vasco los socialistas siempre consideramos que aquella medida planteada por el gobierno de rajoy no resolvía la situación de la crisis que padecía ni en españa ni en euskadi

aquel esfuerzo ante la crisis a quienes ya habían hecho un esfuerzo en los años dos mil diez y dos mil once y el tribunal constitucional

el procedimiento de abono de la paga extra a los funcionarios vascos tras admitir a trámite

el conflicto de competencias planteado por el gobierno central paralizando la paga extra que iban a recibir los funcionarios vascos y el tribunal constitucional mantuvo la suspensión

al considerar que levantar esa medida tendría efectos desfavorables para la necesaria coherencia de la política económica del estado que exigía un carácter unitario

a analizar el fondo del conflicto de competencias entre el gobierno central y el gobierno vasco por esta cuestión y tampoco

de la supresión de la citada paga y como quiera que la normativa estatal dispuso en el año dos mil quince con carácter básico que las distintas administraciones públicas procedieran al abono de dichas cantidades si su situación económico financiera lo hiciera posible o en su caso cuando dicha situación económico financiera lo permitiera y dándose el caso ahora

y las compensaciones financieras para los ejercicios desde dos mil siete al dos mil dieciséis permiten esa disponibilidad de crédito por importe de cuarenta y nueve millónes es por lo que desde la perspectiva presupuestaria y política estamos de acuerdo con que se lleva a efecto

que aprobamos hace seis meses los socialistas vascos apoyamos las leyes de presupuestos tanto para el ejercicio dos mil dieciséis como para el ejercicio dos mil diecisiete presupuestos en los que había considerado un crecimiento moderado de los gastos de personal al servicio del sector público vasco

también de las disponibilidades presupuestarias que podían destinarse a dicho fin aunque también priorizábamos la recuperación del poder adquisitivo de las retribuciones de dicho personal

dejadas de percibir y que aún no se habían recuperado como consecuencia de aquella supresión de la paga extraordinaria

los ingresos obtenidos superan las cifras consignadas en el estado de ingresos del presupuesto para el ejercicio dos mil diecisiete y por lo tanto permiten culminar la recuperación del total de las cantidades

por eso hemos votado a favor esta modificación presupuestaria que nos permite
zanjar aquel conflicto que se generó en el año dos mil doce nada más y gracias eskerrik asko corcuera andrea

mariano rajoy cuando se aprueba el decreto ley que ordenaba retirar la paga extra de diciembre a los funcionarios de todas las administraciones públicas del estado

el gobierno vasco no abonó la paga extra pues porque no quiso o porque no lo intentó lo suficiente porque como sabemos había partido

si no fuera porque los dos gobiernos jugaban en el mismo equipo porque recordemos que había resquicios legales para poder pagar la paga extra de navidad de dos mil doce

el gobierno vasco prefirió hacer amen a las políticas del partido popular en madrid varios juristas que si había voluntad política los funcionarios y las funcionarias vascas podrían haber recibido su salario al completo porque si la administración pública no supera el déficit no se le puede marcar instrucciones

de sus funcionarios y recordar una vez más que la paga extra no es un regalo sino un derecho que fue vulnerado a los funcionarios y a las funcionarias

siete por ciento de la masa salarial de los funcionarios un siete por ciento de la masa salarial que está consolidada en la ley de función pública se escudaba entonces el gobierno de mariano rajoy en que la quita de la paga extra era la única fórmula y sin embargo se ha demostrado que había dinero

pero como siempre el partido popular prefirió meter la mano en los salarios de los trabajadores y las trabajadoras públicas y por eso aunque críticos

hoy con la actuación también del gobierno vasco votamos a favor de que los funcionarios y las funcionarias de la comunidad autónoma de euskadi recuperen extra de navidad de dos mil doce que no nos olvidemos una vez más forma parte del salario íntegro al que tiene derecho todo empleado y toda empleada

heinean nuestro grupo parlamentario ha votado a favor de este proyecto de ley como no podía ser de otra forma

un objeto muy concreto y puntual no estamos hablando ni de cuestiones de la mesa general en la que se habla y se puede hablar de itzarri

de una modificación muy concreta en la que únicamente deja sin efecto una parte de una disposición adicional de la ley de presupuestos vigentes

como consecuencia del mandato del gobierno del estado con este pago el gobierno vasco zanja definitivamente un conflicto originado hace dos legislaturas por el gobierno español con su real decreto ley veinte

esta medida del gobierno de estado supuso una gran sorpresa fue un gran impacto ya que fue adoptada de forma unilateral

e innecesaria principalmente para los empleados y empleadas públicas pero también para el resto de administraciones públicas

ya que se adoptó sin tener en cuenta su situación económica financiera y además y en concreto la del gobierno vasco que en aquel momento sí tenía disponibilidad para haber hecho frente aquel pago pero

a la hora de levantar la prohibición y en ese momento pues no ya no había esa disponibilidad previa

comparte plenamente es que existe una clara tendencia de intervención de la función pública por parte del estado

y en nuestro caso concreto se cercena a nuestro autogobierno

lan egingo zuela madriletik inposatutako mugen ondorio negatiboak gutxitzeko eta halaxe egin du el gobierno vasco desde diciembre de dos mil doce

dos mil doce como ha explicado el sailburu no estaba totalmente limitado y en concreto pues el mismo uno de enero del ejercicio dos mil trece los empleados públicos de esta administración

sin perder ninguna paga extra por lo tanto el impacto en las economías de los trabajadores de esta administración pública de los trabajadores y trabajadoras pues ha sido prácticamente nulo adelanto que por cierto no realizaron

y paralelamente a estos adelantos y en función de la disponibilidad económica financiera el gobierno vasco ha ido abonando parcialmente los

por cuartos la paga extra aquella de dos mil doce en este momento se han pagado ya tres partes y con este proyecto de ley se propone

el pago del último cuarto es ahora precisamente con disponibilidad y con seguridad sin riesgos para el equilibrio presupuestario cuando

el pago de esta parte cuando los ingresos obtenidos han sido superiores a las previsiones tal como se ha ratificado también en el consejo vasco de finanzas públicas recientemente en este mismo en el mes de octubre

entonces bueno voluntad ha habido siempre pero las decisiones hay que adoptarlas desde el rigor y la responsabilidad el impacto económico de esta medida se estima

perfectamente en el expediente es un expediente claro completo correcto que tiene todos los documentos e informes que tiene que tener de legalidad económicos memoria

y todos los informes son favorables por lo tanto no es correcto sembrar dudas sobre dicho expediente horregatik guztiagatik

lo que venía en el tocho que primero intervenían los enmendantes pero bueno

uno parece que no ha considerado que la debía de defender en el pleno

supongo que pero me referiré desde luego a las enmiendas de otros grupos y en este caso la única enmienda

con la presencia de las cooperativas y en este caso de la economía social en un órgano importante como es el consejo de administración de spri

que existía desde hace tiempo el hecho de que las cooperativas fundamentalmente aunque vamos a hablar de las empresas de economía social donde las

no estaban representadas en un ámbito donde se hablaba de industria donde se hablaba de economía donde se hablaba de empresas

vuelvo a decir que impulsa la labor y que apoya la labor de las empresas vascas en todos los ámbitos los grupos enmendantes se referían a que en vez de poner representante de la economía social pusiese representante de konfekoop yo entiendo y también konfekoop que es la confederación vasca de cooperativas

en relación con que sea la persona que tengan que el representante la representante que tenga que ir a ese consejo sea alguien de las cooperativas y que en ese sentido sin duda será de konfekoop que es quien aglutina la inmensa mayoría

potentes cooperativas de euskadi está claro que el gobierno debe de enviar como representante de la economía social al consejo de dirección de la spri que quiero recordar que antes se llamaba sociedad para la promoción y reconversión industrial y hoy se denomina

debe de enviar sin duda alguna alguien de konfekoop pero también es de técnica legislativa el hecho entendemos de que una ley no ponga

a ámbitos privados de organización económica en el llamamiento público que hace esa ley

es importante es decir no se entendería que una ley que regula cuestiones de representación en el entramado público hable de confebask

hablará de la representación de las organizaciones empresariales o de los agentes económicos como tampoco se entiende que una ley de nombres y apellidos

sindicales más representativas y además es que hay que decir que en esta ley proposición de ley ley que será seguramente

el tema cooperativo ya se identifica en la exposición de motivos de la proposición de ley el parlamento vasco dice en la exposición de motivos valorando de forma muy positiva la contribución

como elemento fundamental insta a las instituciones públicas vascas a profundizar en el reconocimiento del movimiento cooperativo vasco y de la economía social en general dando los pasos necesarios para lograr

en los órganos e instituciones que articula las políticas sociales y económicas de euskadi bueno pues eso es lo que se consigue desde luego con el artículo único de esta ley que se aprobará en breve y además se convierte además al cooperativismo en referencia de las organizaciones de economía social

el representante del movimiento cooperativo pero será el representante de la economía social así que será un poco

de las empresas de economía social que recordemos que además

están otro tipo de empresas las cofradías de pescadores las mutualidades y otro tipo de asociaciones y fundaciones con actividad económica

nombre a un representante de la economía social lo ligamos estrictamente con la cooperativa en el consejo de administración de la sociedad de transformación cuyos objetivos y funciones tienen una incidencia además

una directa incidencia sobre el fomento sobre la promoción la internacionalización la expansión

o sea que estamos ante una oportuna reforma después de que una ley como la ley de

que tiene treinta y seis años y que ahora también

está en un proceso de reforma en lo relativo a la internacionalización hemos visto estos días y además el gobierno

en el exterior será desde ahora la agencia vasca de internacionalización entonces qué pasa pues que la economía social que hasta ahora no formaba parte de sus órganos

y sus formas jurídicas fundamentalmente las cooperativas también están internacionalizadas y eso es un elemento fundamental y que va a ser enriquecedor

que adopta la spri a partir de ahora y es un motivo más para que participen en estos ámbitos de decisión de apoyo de incentivo y de impulso a las empresas vascas yo creo que es una ley pequeña es una ley corta es una ley breve es una ley de artículo único pero una ley importante yo creo que en el sentido que hemos hablado muchas veces y además desde las

el estar presentes en ámbitos en organismos en órganos de dirección de políticas que hablan de economía que hablan de internacionalización de empresa de industria y en ese sentido pues yo creo que hila perfectamente con las necesidades es un avance

clásica de las empresas cooperativas y de economía social de estar en esos órganos y en esos ámbitos de decisión y desde luego que subsana un déficit yo

hemos dado un paso adelante en relación con esta cuestión quedan muchos otros en relación con la economía social y su presencia en ámbitos de decisión importantes en este país pero en cualquier caso es un paso más yo animo a los grupos valoro como grupo proponente en su día

a un acuerdo con el grupo socialista y con el grupo nacionalistas vascos en relación con este texto yo animo

a que dé el paso definitivo y apoye esta iniciativa él ya sé que abría la puerta a que fuese más de un representante probablemente

mínimo uno pero en cualquier caso yo creo que estamos dando un paso importante y también hemos recibido el placer y desde luego el agrado

y desde luego también a la hora de hablarlo con el gobierno el compromiso de que

dirección muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak

evidentemente nuestro grupo desde el principio apoyó la proposición de ley

de la de justicia que la economía social entrase a formar parte de uno de los ámbitos de los muchos ámbitos en los que todavía no está y este era uno de ellos y es suficientemente importante

por qué hemos mantenido nuestra enmienda

no solo un representante sino dos deberían de estar de la economía social al menos y aquí tengo que decir y me gustaría que constase en acta que nuestra enmienda tiene una errata y es que dice que se incluirá como mínimo un representante cuando quiere decir se incluirá como mínimo dos representantes de la economía social de los cuales al menos uno en representación de konfekoop

a otros muchos campos como la internacionalización la innovación etcétera que no solamente hacen referencia a empresas industriales sino a empresas de todo tipo y entre esas empresas también a las de la economía social

por un lado porque el peso de la economía social en la economía vasca ha ido creciendo y a día de hoy el dieciséis por ciento de las empresas vascas son empresas de la economía social

y además en el mundo de la economía social convive una doble realidad por un lado tenemos

pequeñas cooperativas de la economía social a las que habitualmente hemos denominado como el tercer sector esa enorme diversificación hace que entendiéramos que al menos debería haber una representación de cada una de esas realidades a día de hoy

no ha sido posible que se incluyera nuestra consideración y bueno pues lo asumimos con deportividad pero entendemos que tenemos que someter

de esta cámara nuestra enmienda por si resultase de interés

mantenemos nuestra enmienda con la salvedad que he dicho de la errata que aparece y sí tengo que decir que bueno no nos opondremos obviamente a la aprobación del dictamen de la ponencia porque entendemos como he dicho anteriormente que es importante

sí gracias presidenta bien los socialistas vascos hemos votado esta modificación de la ley de la spri que se nos proponía porque

y en segundo lugar que se establece el procedimiento para realizar coordinadamente dicho nombramiento en base a las responsabilidades que se ejerzan en el gobierno vasco

y con ocasión de la toma en consideración de esta proposición de ley los socialistas vascos ya justificamos entonces nuestro voto a favor asentándolo en dos aspectos primero

que resulta coherente además con el acuerdo que adoptamos en esta cámara el quince de octubre de dos mil diez aquel acuerdo instaba a las instituciones públicas vascas a profundizar en el reconocimiento del movimiento cooperativo vasco y de la economía social dando así los pasos necesarios para lograr su presencia en los órganos e instituciones que articulan las políticas sociales y económicas de euskadi y en segundo lugar porque resultaban adecuadas las características de la economía social en euskadi respecto a la economía vasca en general en las áreas principalmente

se constituyó en mil novecientos ochenta y uno como uno de los principales instrumentos a través de los que el gobierno vasco desarrollaba la política industrial en relación sobre todo a la promoción

a fin de que esta alcanzase el suficiente grado de competitividad

no es menos cierto que hay tres características principales de la economía social vasca que son de especial interés con relación a las acciones que ahora mismo está llevando

como pilar básico de la competitividad la apuesta por la innovación es un riesgo y una apuesta comparativamente más consolidada entre las empresas de la economía social que en el conjunto de la economía de la comunidad autónoma vasca y de dos mil doce a dos mil catorce la proporción del colectivo empresarial adscrito a la economía social

cuatro coma seis puntos porcentuales por encima de la media general de las empresas vascas otro factor era el tema del empleo otro factor era

y esto nos hacía entender que era necesario que la economía social

en esos consejos de administración que promovían estos ámbitos de innovación empleo reactivación económica y se da una quizás una paradoja que no queríamos tampoco dejar de lado y es el hecho que se plantea en el proyecto de ley de presupuesto que recientemente ha entrado en la cámara para el ejercicio de dos mil dieciocho se plantea en esa ley de presupuestos la transformación de la spri de la sociedad de transformación competitiva

de derecho privado debido a una relectura de los instrumentos más adecuados para desarrollar los planes de emprendimiento industrialización e internacionalización

incompatible con el acuerdo que hemos adoptado hoy aquí y que bien podremos hacerlo efectivo a través de la propia ley de presupuestos del ejercicio dos mil dieciocho

hagamos valer ese acuerdo que ha costado llegar porque no ha sido una iniciativa fácil que ha tenido un recorrido sencillo pero bueno ya está lo hemos aprobado y creo que podemos hacerlo perfectamente compatible con lo que plantea el proyecto de ley de presupuestos para el dos mil dieciocho

bertatik bai muy breve por dos razones una porque así

al hablar poco de ser sometido a cualquier proceso judicial y en segundo lugar porque no hay mucho de qué hablar

una solicitud del grupo popular para que la economía social

en el consejo de administración de spri y hoy hemos aprobado un texto de ley que dice

incluirá un representante de la economía social luego hemos cumplido
lo que se solicitó compromiso cumplido muchas gracias eskerrik asko tellería jauna